buenas tardes a todas y a todos miembros del gobierno señor lehendakari yo le pido señor lehendakari que haga el favor

y observe la situación en la que se encuentran los ciudadanos vascos

en la piel de la ciudadanía vasca y observe cuántos ciudadanos cuántos miles de ciudadanos están en peor situación de la que se encontraban hace exactamente

cuántos problemas y cuáles ha resuelto usted durante este último año o mejor dicho cuántos problemas han resuelto ustedes es decir

su gobierno y quienes le han venido dando apoyo durante este último año cuáles son los problemas concretos que usted ha ayudado a resolver durante el último año

y cuánta gente está hoy igual de mal o incluso peor un año puede decirles algo más allá de decir que estamos mejor que en el resto de españa qué hoja de servicios puede mostrar usted a la sociedad vasca zertan gaude

y miles de ciudadanos vascos que a día de hoy están peor que hace un año y usted durante la mañana de hoy ha mostrado una gran insensibilidad para con todos ellos hoy tenemos ciento sesenta y nueve mil ciento ochenta y ocho vascos que no tienen trabajo

una tasa de paro del dieciséis por ciento una tasa de paro juvenil del cuarenta y cuatro por ciento seis de cada diez parados vascos lleva un año sin empleo solo el nueve por ciento de los nuevos contratos son indefinidos y además estamos asistiendo a una precarización continua de las condiciones laborales de los trabajadores se ha producido durante todo este año un incremento de la pobreza se ha producido durante este último año un incremento de la pobreza

otros treinta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro viven en familias con falta de recursos

ha hecho oídos sordos a la petición de este parlamento y del propio ararteko de presentar un plan de lucha contra la pobreza y además se ha producido en este último año un incremento de la pobreza energética su gobierno ha hecho oídos sordos

medidas concretas contra la pobreza energética en este último año se ha producido un incremento de la desigualdad se han seguido produciendo desahucios y cientos de jóvenes vascos se han visto obligados a salir de euskadi para buscar el empleo que aquí no encuentran además se consolida una nueva clase social personas que trabajan pero no llegan a final de mes

los gastos básicos un once por ciento más que en dos mil doce y el veinticuatro coma dos por ciento de los hogares es incapaz de afrontar los gastos extras un cuatro coma cuatro por ciento más que en dos mil doce qué les dice usted a estos ciudadanos que están claramente en peor situación de la que se encontraban

qué mensaje les puede trasladar además de decir que estamos mejor que el resto de comunidades autónomas en nuestra opinión todo esto dibuja un panorama insostenible económica y socialmente del que usted es directamente responsable no solamente ha sido incapaz de revertir la situación sino que la ha empeorado

y a través de recortes sociales tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario o de las ayudas sociales es decir los ciudadanos vascos están peor un año y se ha perdido un año para tomar las medidas necesarias además sigue creciendo la deuda pública ha crecido un treinta y uno por ciento desde que usted llegó a la lehendakaritza alcanza los nueve mil quinientos veinticuatro de euros usted todo esto lo ha obviado hoy por la mañana obvia los problemas reales de la ciudadanía obvia a la gente que peor lo está pasando obvia

se compara con el resto de españa pero olvida que en euskadi no se crea empleo se incrementa la pobreza se incrementa la desigualdad y se incrementa la precariedad laboral todo esto usted lo obvia como si usted

este año usted ha demostrado y a los hechos me remito y a los datos me remito una gran incapacidad para resolver los problemas reales

y durante la mañana de hoy ha mostrado una enorme insensibilidad al no reconocer la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos vascos miles

no se ha dirigido expresamente a ellos para decir que ellos son el motivo fundamental y la razón fundamental de este gobierno no les ha trasladado esperanza no ha hablado usted de esa gente que tan mal

toda esta situación evidentemente es producto de las políticas que se han impulsado desde europa de las que ha impulsado el gobierno de españa pero por supuesto de las que usted está

responsabilidad suya y de quienes le han dado apoyo y sustento por cierto bien

bien firmando pactos que no han tenido y no tienen otro objetivo que blindar partidistas hace un año usted estaba solo este último año le han acompañado pero lo cierto es que hay miles y miles de ciudadanos vascos que siguen igual de solos que como estaban hace un año y hace dos en todo caso es usted el principal responsable de los problemas que tiene euskadi

dos años después su balance señor lehendakari es realmente lamentable bi urte geroago penagarria da zure balantzea gaur

usted puede que haya estado más cómodo en este último año pero los ciudadanos están peor por tanto tenemos desempleo desempleo juvenil desempleo de larga duración

incremento de la pobreza vascos que tienen que irse al exterior porque aquí no encuentran empleo y seguimos teniendo desahucios resolver estos problemas

a ellos debería usted haberse dedicado a crear empleo a impulsar la actividad económica a poner en marcha las inversiones productivas que tiene paralizadas

a impulsar las reformas que euskadi necesita esta era su principal tarea rescatar a los ciudadanos de la crisis económica en la que se encuentran atender a los que peor lo están pasando impulsar políticas y medidas y reformas para hacer todo esto posible en lugar de impulsar nuevos

crear empleo estable digno y de calidad defender los servicios públicos y el estado del bienestar sin embargo ni ha sido capaz ni ha querido llevarlo a cabo no solamente no ha sido capaz de resolver ni uno solo de los principales problemas que tiene euskadi sino que incluso ha creado problemas nuevos en osakidetza hay huelgas paros y manifestaciones convocadas

laboral de los últimos años y entre los funcionarios públicos en fin se encuentran soliviantados por las medidas que ha tomado y las nuevas con las que les amenaza

ni una sola de las actuaciones que nosotros consideramos indispensables urgentes y que venimos reclamando en los últimos años ni reforma del entramado institucional vasco

ni una sola medida para reducir duplicidades ineficiencias o desigualdades producidas por nuestro caduco entramado institucional vasco sobre la cuestión

ni racionalización del sector público o societario esa administración paralela creada por el partido nacionalista vasco durante largos años mantenida por el gobierno lópez durante tres años y medio y que ustedes se niegan a racionalizar ni una sola medida en este último año

no se han presentado los resultados de ese supuesto plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que ustedes pactaron hace un año con el partido socialista dónde están esos resultados

ciertamente triste ustedes acuerdan y pactan para repartirse cargos y defender sus propios intereses pero nunca lo hacen para llevar a cabo estas reformas viene bien recordar qué es lo que decía

un año exactamente decía en el debate de política general y en relación al pacto

decía expresamente hay un antes y un después de la firma del acuerdo del partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi

un gran impacto es la mejor noticia política en mucho tiempo pues bien hay miles y miles de ciudadanos vascos que están peor que hace un año

ha servido y yo un servidor en aquel debate de política general yo efectivamente decía en nuestra opinión estamos ante un matrimonio

es un pacto para dejar las cosas básicamente como están no hay ambición ni espíritu transformador un año después creo que no ha perdido vigencia

dicho pacto un año después siguen pendientes todas las reformas que nosotros llevamos años defendiendo y hoy señor lehendakari se las volvemos a exigir

murriztu nada de esto se ha hecho a ustedes le han aprobado los presupuestos y han firmado un pacto con usted por puros intereses partidistas

cambie los ciudadanos están peor que hace un año usted puede que esté o haya estado más acompañado pero los ciudadanos

dicho esto señor lehendakari yo le pido también que haga una reflexión en relación a un asunto que no ha sido tratado durante la mañana de hoy por usted qué le parece a usted la corrupción política que existe en euskadi

qué le parece la corrupción que existe en euskadi y las corruptelas que existen en euskadi no ha dicho nada sobre la cuestión

apenas unos días el fiscal superior del país vasco haya dicho lo que todos sabemos que en euskadi hay corrupción

de presunta corrupción localizada a nivel municipal y que afecta municipios qué le parece a usted que haya amigos del partido nacionalista vasco cargos del partido nacionalista vasco que hayan sido imputados que hayan venido

sin haber ido a trabajar un asunto que traje yo aquí hace algunos meses por lo cual se me insultó desde la bancada del partido nacionalista vasco qué le parece a usted el caso de miguel o qué le parece a usted el dinero el dinero que se ha derrochado

en fin cuéntenos usted algo en relación a la corrupción política qué medidas va a impulsar este gobierno para luchar más y mejor contra

tampoco ha dicho nada en relación a la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos vascos víctimas de prácticas bancarias abusivas ellos también son ciudadanos vascos nada ha dicho usted en relación a esa cuestión señor lehendakari no solo no resuelve los problemas de los ciudadanos no solo crea problemas nuevos no solo calla ante la corrupción no solo no mueve un dedo para impulsar las grandes reformas que euskadi necesita no solo impulsa

nos introduce gratuitamente en la senda de un nuevo estatus cuyo contenido se niega a explicar o a concretar en sede parlamentaria

de una inmensa cobardía otra vez en fin dos adjetivos que califican la trayectoria del partido nacionalista vasco en relación a esta cuestión equidistancia y cobardía e irresponsabilidad

ni qué es exactamente lo que quiere ni qué pasos concretos va a dar para alcanzarlo ni con qué apoyos cuenta ni muy importante si piensa usted vulnerar la legalidad vigente tras hablarnos de un nuevo estatus de una nación vasca en europa del cumplimiento íntegro del estatuto de gernika de la actualización del autogobierno

ahora usted quiere seguir el camino de escocia y aunque no concreta nada que usted hable de escocia ya es motivo suficiente para decirle que es una

absoluta quiere esto decir que usted quiere la independencia el modelo escocés es el suyo esto quiere decir que el partido nacionalista vasco quiere la independencia lo que tienen que hacer en el caso de que así sea es proponerlo directamente para que los ciudadanos vascos

el partido nacionalista vasco incapaz por lo tanto de resolver los problemas que tienen los ciudadanos ahora se fija usted en escocia con todo lo que ello implica es decir en el colmo de la irresponsabilidad más absoluta

en la senda de la división y del enfrentamiento porque qué sentido tienen pretender separarnos de nuestros vecinos y fragmentar la sociedad

tiene en la europa actual y en el siglo veintiuno pretender levantar nuevas fronteras para qué sabe usted cuáles serían las consecuencias

en la europa actual en el mundo globalizado de hoy donde todos los países y todos los políticos razonables lo que pretenden es derribar fronteras derribar muros usted viene aquí a plantearnos justamente todo lo contrario solucione por lo tanto los problemas de la gente no cree problemas nuevos a la ciudadanía

tendrá usted y su gobierno enfrente a upyd si lo que pretende es saltarse la legalidad vigente que es lo que efectivamente parece vulnerar la constitución española

o de los vascos con el resto de los ciudadanos españoles harresi berriak muga berriak ez dira eraiki behar suntsitu baizik nuestro discurso en este asunto seguirá siendo muy claro si se lo volvemos a repetir

defienden es una falacia la consulta a la que ustedes aspiran es inaceptable la ciudadanía no se puede fraccionar la soberanía en el conjunto de los ciudadanos españoles y el futuro del país lo decidimos entre todos el modelo territorial del país del estado de españa lo decidimos el conjunto de los ciudadanos españoles

su derecho a decidir consiste realmente en privar a millónes de ciudadanos de ese derecho porque como le digo el derecho a decidir correspondería en todo caso al conjunto de los ciudadanos españoles tenga en cuenta por lo tanto estos principios tenga en cuenta la legalidad vigente en todo caso nosotros en fin no vamos a

ante cualquier tipo de propuesta que puedan plantear los partidos nacionalistas es decir que no tenemos miedo y no nos vamos a meter debajo de las piedras no vamos a pertenecer a ninguna minoría o mayoría silenciosa vamos a hablar claro y vamos a explicar cuáles son

y evidentemente la constitución española puede reformarse y puede reformarse a través de los procedimientos legales establecidos a través de esos procedimientos legales establecidos puede reformarse la constitución española de hecho nosotros lo hemos propuesto de hecho nosotros lo llevamos defendiendo unos cuantos años nosotros queremos una reforma de la constitución española para reformar el estado autonómico para acabar con las duplicidades con las ineficiencias con las desigualdades y para ir hacia un estado federal pero un estado federal simétrico

que garantice la máxima igualdad posible entre el conjunto de la ciudadanía española un estado federal dentro de una europa federal esta es y esta no es ninguna oferta al mundo nacionalista es una propuesta que tiene como objetivo mejorar la vida de los ciudadanos del conjunto de los ciudadanos

los nacionalistas son insaciables es imposible alcanzar ese objetivo y tampoco lo pretendemos de hecho alcanzarlo o pretender alcanzarlo sería perjudicar a una mayoría de ciudadanos pero en todo caso esta es nuestra

se puede reformar la constitución española nosotros queremos reformarla trataremos de utilizar los mecanismos

habilitados para tal fin pero en todo caso para

mejor haya más igualdad más solidaridad y la vida de la gente mejore ya digo

a medidas soberanistas porque lo que

no es más nacionalismo sino más igualdad y más solidaridad y más democracia esto es lo que realmente necesita euskadi el conjunto del país y el conjunto de los ciudadanos europeos no se olvide que usted tiene que respetar la constitución española

por lo tanto abandone su equidistancia abandone su cobardía y diga exactamente qué es lo que quiere el gobierno a dónde quiere llevar a euskadi en los próximos años

usted ha hablado también de pacificación nos queda lograr la derrota definitiva

duintasuna eta terrorismoaren biktimen duintasuna babestu behar dugu estos siguen siendo los objetivos fundamentales que nosotros defendemos lograr la derrota definitiva e incondicional de eta ciertamente llama la atención que usted

haya dedicado más tiempo más ganas más esfuerzos haya incluso alzado la voz para pedir a los diferentes partidos políticos democráticos que

y de convivencia y sin embargo no haya dicho nada a aquella bancada de allí enfrente en relación

que es exigir a eta su disolución definitiva e incondicional ha llamado poderosamente la atención que usted pida a los partidos políticos democráticos que vuelvan a la ponencia de paz y de convivencia y sin embargo no haya dicho usted a la izquierda abertzale a eso que se llama la izquierda abertzale que lo que tiene que hacer es romper definitivamente algo tan sencillo como que

su disolución definitiva e incondicional habla usted ha hablado hoy ha hablado en los últimos tiempos de medidas

llevar a cabo la reinserción de los presos de eta apenas habla usted ya de las víctimas del terrorismo se centra permanentemente

y olvida permanentemente hoy también lo ha olvidado la situación en la que se encuentran las víctimas del terrorismo en todo caso yo le digo señor lehendakari que no puede haber sin cumplimiento de penas por parte de los presos de eta deben cumplir las penas por los crímenes cometidos deben cumplir las penas

beneficios penitenciarios sin cumplimiento estricto y riguroso de los requisitos establecidos en el código penal y en el reglamento penitenciario

desvinculación definitiva de la banda terrorista petición de perdón a sus víctimas asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración fehaciente con las autoridades y la justicia que permita resolver los crímenes cometidos por eta pendientes de resolución que son más

a las víctimas del terrorismo acérquese usted a ellas escúchelas pregunte cómo se encuentran qué necesitan creo que esto es lo que usted no ha hecho durante los últimos tiempos y hoy aquí se lo vuelvo a exigir las víctimas del terrorismo las que necesitan de nuestro apoyo y expresamente del apoyo del gobierno vasco porque se han sentido abandonadas en los últimos tiempos y esa política por lo tanto hay que cambiarla en definitiva señor lehendakari

avanzar no es que usted disfrute de consenso político sino solucionar los problemas de la ciudadanía esto es avanzar políticamente tomar medidas llevar a cabo actuaciones para mejorar la vida

no llame usted tanto al consenso para que todo siga igual mejorar o avanzar

avanzar en política es que los ciudadanos vivan mejor y en concreto y especialmente los ciudadanos que peor lo han pasado y lo están pasando en los últimos tiempos en euskadi avanzar políticamente no es que usted se sienta más cómodo o que tenga más acuerdos o que los presupuestos se aprueben avanzar políticamente es resolver

señor lehendakari usted ha demostrado una enorme insensibilidad para atender los problemas reales de los ciudadanos usted ha mostrado una inmensa incapacidad para resolver los problemas fundamentales de la sociedad vasca y por cierto niega que estamos peor que hace un año lo niega

además no quiere no ha querido impulsar durante los últimos tiempos ninguna de las reformas que euskadi necesita no ha dicho nada en relación a la cuestión y eso que firmó un pacto político que supuestamente era para avanzar en algunas de esas políticas

no quiere impulsar las reformas por lo tanto que euskadi necesita usted realmente ha seguido la senda de otros gobiernos

innumerables e injustos recortes sociales que niega permanentemente

pero que están ahí y que afectan a miles y miles de ciudadanos básicamente lo que usted ha hecho impulsar recortes sociales en lugar de poner en marcha

necesita usted nos quiere llevar por la senda además del enfrentamiento y la división a través de un nuevo estatus que no termina de concretar

y yo le digo que no necesitamos más nacionalismo

no necesitamos más fronteras sino menos no necesitamos más desigualdad sino más igualdad no necesitamos menos solidaridad sino es decir no necesitamos más nacionalismo sino menos es decir más democracia más igualdad y más solidaridad en fin señor

que sepa que sí fuera por nosotros usted dejaría de ser lehendakari hoy mismo gracias eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko presidente andrea arratsalde on guztioi es curioso lehendakari que después de los debates que su gobierno alimenta durante toda la legislatura ante la sociedad hoy venga usted a esta cámara precisamente

esos mismos que ustedes promueven en el día a día de su gobierno

que es donde corresponde y a diferencia de usted considero que nuestra obligación es hablar primero de política de nuestro modelo para euskadi y luego de la situación económica y los retos a los que nos enfrentamos uste dut euskaldunok hemen eusko legebiltzarrean gutaz

subrayando algo obvio pero no menos necesario euskadi es una realidad social política y económica

y lo es desde hace treinta y cinco años en estos treinta y cinco años de democracia

como nunca en la historia hoy treinta y cinco años después nadie podrá negar que euskadi tiene el mayor nivel de autogobierno de los pueblos de europa

aspiran y treinta y cinco años es una edad como para afrontar la vida con madurez

ese es el tiempo al que nos enfrentamos hoy los vascos y podemos afrontar nuestro futuro

de la queja o hacerlo desde la madurez que es lo que yo defiendo hemos vivido y padecido una infancia y una adolescencia ciertamente complicadas

traumáticas diría yo que nos ha afectado mucho y nos ha marcado mucho con conductas agresivas desobedientes y desafiantes que iban más allá

el caso es que a los treinta y cinco años creo que ha llegado el momento de que la política vasca alcance definitivamente esa madurez que yo defiendo esa madurez para responder

al conjunto de los vascos yo sí quiero iniciar esta nueva etapa de madurez en nuestra corta vida institucional y creo que esa madurez se alcanza

y tratemos de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y su gobierno no hoy usted qué casualidad lehendakari

en el no me dejan en la rebeldía en la inmadurez porque superarse no es hacerse distinto lehendakari es hacerse

y eso lo lograremos cuando dejemos de competir entre nosotros mismos y de compararnos permanentemente deje ya lehendakari de pensar en españa como el culpable y céntrese en lo nuestro que es mucho y bueno

y verá como nos va mejor le propongo enfocar todo nuestro potencial vasco en dar lo mejor de nosotros mismos y deje

de inferioridad o superioridad los vascos hemos llegado a la madurez y queremos disfrutarla con todo lo que tenemos que es mucho

que no conduce más que a frustraciones colectivas innecesarias

decía daniel innerarity algo que es básico asumir por parte de quienes nos dedicamos a la política la política es un lugar donde hay que tramitar asuntos muy complejos

también en el terreno de los sentimientos y de las identidades porque en el fondo la política es un ejercicio pragmático para gestionar ilusiones

quien no sea capaz de soportar un cierto nivel de frustración es que no vale para esto porque en política no es posible conseguir lo que uno quiere

las frustraciones las de cada uno de los que estamos aquí representando diferentes opciones no puede volcarse como un conflicto político ante el conjunto de la ciudadanía sino como algo consustancial a la política si la entendemos como la entiendo yo como el escenario o el ejercicio donde se integran las aspiraciones de todos los que componemos esta sociedad le hago esta reflexión porque en el discurso de esta mañana ha vuelto a plantear como un problema para los vascos su relación con españa

recentralizadores que no se corresponden con la realidad por mucho que ustedes se empeñen y creo que los vascos nos merecemos vivir

creo que los vascos nos merecemos superar esa tensión que su gobierno traslada en el día a día entre otras cosas

no está ahí si no en como los vascos nos adaptamos a un mundo cada vez más global y como usted en la medida de sus capacidades lidere esta sociedad a escala global cosa que usted nos ha demostrado esta mañana no tiene la valentía para afrontar zure proiektua independentzia bada esan

la identidad vasca no necesita la independencia la cultura vasca no necesita la independencia la economía vasca no necesita la independencia la mayoría de la sociedad vasca no quiere la independencia y usted lo sabe la identidad vasca está reconocida y se ha desarrollado y fortalecido como nunca lo había hecho en su historia la cultura vasca está reconocida a partir de grandes escritores vascos en euskera

premios nacionales de literatura la economía vasca cómo va a necesitar la independencia en un mundo global y competitivo

la mayoría de la sociedad vasca no quiere la independencia

para qué no entiendo ese empeño por encerrar a nuestra sociedad en un debate que tiene más que ver con la sublimación de sentimientos mire

del separatismo de su ideología no es su legitima aspiración al orgullo sobre la nacionalidad sino la insistencia en dotarse de un estado independiente

la creencia en que los vascos debamos elegir entre euskadi y españa

siempre hemos rechazado sentimos lealtad hacia ambas deseamos ser vascos y españoles en el orden que queramos y no necesariamente elegir una única parte de nosotros mismos pero en cualquier caso

que si sigue deslumbrado por lo sucedido en escocia y está convencido de que ese es el camino porque no les vale con el nivel de autogobierno que tenemos los vascos siga el mismo camino de lealtad constitucional y su respeto a los procesos democráticos porque los escoceses han dado un ejemplo de cómo de puede hablar de todo dentro de un régimen constitucional

de cómo se puede conducir un debate sin violentar las conciencias y las voluntades de los ciudadanos si su proyecto es la independencia

y siga el camino de los escoceses pero sígalo de verdad primero plantéelo de forma clara y prioritaria en su programa electoral sin ambigüedades

gane la aprobación en el congreso de los diputados como los escoceses han ganado en la de su parlamento y finalmente desarrolle un debate una campaña basada en argumentos pero siempre desde el reconocimiento de que tan vasco

como el que sí por si queda alguna duda que le he visto que se reía

es para empezar negar ese debate en esta cámara impidiendo como han impedido que ese debate se produzca aquí

no nos da miedo el debate de la independencia a mi grupo no le da miedo ese debate es más estamos deseando contraponer dos modelos diferenciados para el futuro de esta sociedad

y el proyecto común y la colaboración que estamos convencidos es el mejor

euskadiren independentzia nork eragozten dizue hori egitea lo que no me parece honesto lehendakari

como hace usted en esta cámara y como hizo usted en la última campaña electoral eso sí para ese mismo domingo conocido los resultados

el grito que se escucha lo que no me parece honesto lehendakari

y tener previsto un calendario fijado de antemano con sus conclusiones

después de las selecciones del dos mil quince lo han dicho ustedes así y creemos que es una falta de respeto a este parlamento y una nueva demostración de deslealtad creo sinceramente que todos estos juegos todos estos cálculos tienen los días contados por obvios

para jugar con tanta frivolidad con el futuro de nuestra sociedad sabe por qué le digo esto de la frivolidad porque una sociedad

y con la alarma puesta en si vamos a ser capaces de recuperar el empleo industrial una sociedad que desde el año dos mil once

el perfil y los motivos de las personas que se van una sociedad con uno de los índices de natalidad más bajos de europa nueve nacimientos por cada mil habitantes una sociedad con quinientos veinticinco mil pensionistas con las más altas de españa y que cuenta uno coma sesenta y siete trabajadores en activo por cada pensión y una sociedad con apenas dos millónes de habitantes está claro que presenta tal debilidad estructural que hace inviable cualquier aventura en solitario o cree usted que euskadi puede ser viable como nación independiente con estos datos que le he dado sin embargo podríamos seguir el modelo de baviera en alemania es decir

con todo nuestro nivel competencial y para eso no necesitamos nuevos estatus nuevos encajes ni nuevos pactos con españa sencillamente porque ya los tenemos porque la sociedad vasca con el pnv a la cabeza pactó a finales de los años setenta

que es lo que hoy nos permite avanzar sobre todo lo bueno que tenemos y nuestro principal valor el de una sociedad esforzada seria altamente competitiva en capital humano y social con su personalidad diferenciada y propia de la que nos sentimos plenamente orgullosos

y todo ello puede y debe ser estimulado gracias a lo que ya tenemos y no tienen otros

esa combinación de autogobierno insólito en europa esa singularidad reconocida en el estatuto respaldado por la inmensa mayoría de una sociedad tan plural como la nuestra esa capacidad financiera recaudatoria y la cobertura de un país como españa que cubre nuestra debilidad estructural con una solidaridad

reconocer y poner en valor nos parece la mejor combinación posible para progresar y movernos por el mundo dejando satisfecha a la inmensa mayoría de esta sociedad tan diversa y plural para qué buscar

usted ni siquiera concreta ni define competir en un mundo global ser un actor en europa es una tarea dura y difícil

trabajan duro desarrollan su capacidad de creación de nuevas iniciativas y fomentan la cohesión y la solidaridad dentro de ellas y en relación con su área de influencia

y la que nos va a permitir fortalecer nuestra identidad nuestra cultura nuestra economía

y es que lehendakari el autogobierno no es un fin el autogobierno es una herramienta fabulosa que tenemos en nuestra mano

y ese autogobierno y eso también lo sabe el lehendakari está reconocido en la constitución de mil novecientos setenta y ocho

es gobernar para todos los vascos no hace falta que se lo recuerde dividir y fragmentar esta sociedad no está entre sus obligaciones que se produzcan tensiones con madrid o con bruselas es lo normal en cualquier tipo de convivencia y en la política también

las focalizan hacia el mismo lado hacia madrid como si fuera su bálsamo perfecto es curioso porque

quién defendió el concierto económico cuando bruselas dijo que no le gustaba

el concierto económico en bruselas quién protege nuestra capacidad impositiva y recaudatoria españa sí la constitución sí si bruselas ampara nuestro concierto económico es porque lo ampara la constitución de uno de sus países miembros

no pasa nada por qué en lugar de reconocerlo siempre siembran dudas por qué se empeña en hacer ver que este partido no defiende el concierto económico mi grupo

el gobierno de españa a pesar de las provocaciones de algunos de los miembros de su gobierno y del partido nacionalista vasco y porqué no reconocerlo también de mi partido siempre defenderá

que a nadie le quepa la menor duda más allá de todo este debate sobre lo que somos sobre lo que queremos ser eterno debate público alcancemos la madurez de una vez

valorar su gestión y ofrecerme para mejorar las cosas

el paro y el relanzamiento de nuestra economía la solidaridad con los que más están padeciendo estos tiempos de cambios y garantizar lo que llamamos el estado de bienestar

del crédito perdido por la indecente corrupción y los abusos de poder cuestión a la que usted ni siquiera se ha referido esta mañana

gobernu hartan egon ziren irregulartasunak eta erabakiak gainditzeko todo esto que estamos viviendo lehendakari que está padeciendo la ciudadanía

al menos debería servirnos para extraer algunas lecciones para el futuro la primera de ellas que tenemos que innovar en el gobierno vasco

mucho hablar a usted de innovación yo comparto que es necesaria

la innovación pero por qué siempre hablan de innovación hacia fuera exigiéndosela a los demás en qué innovamos nosotros usted lehendakari

de la sociedad será necesario innovar en la gestión porque difícilmente vamos a poder abordar retos tan necesarios inmediatos y costosos

de euros una deuda que en lo que va de año su gobierno ha incrementado en mil doscientos cuarenta y cuatro millónes

adaptarla a la innovación atender a quienes no pueden más modernizar la educación

fomentar la natalidad e invertir los problemas estructurales si no define con toda crudeza qué es lo importante y qué es lo secundario

qué es necesario corregir y analizar y dónde ve vital apostar económicamente

se lo digo porque me sorprende el criterio por el que su gobierno destina trescientos treinta y cinco millónes de euros a la agenda estratégica del euskera y tan solo diecisiete a las ayudas para conciliar la vida laboral y familiar trescientos treinta y cinco millónes al euskera

toda una carta de presentación de cuáles son sus prioridades y su gobierno que ha cortado en seco las ayudas porque no hay más presupuesto y de eso se lamentaba usted esta mañana para ellas

que ya tenían previsto que ya habían hecho una previsión

por si fuera poco su gobierno ha dicho que se debe abrir un debate sobre las ayudas a la conciliación familiar y laboral también a las ayudas

a las familias por tener hijos porque no hay recursos suficientes dicen y que hay que ver cuál es su utilidad y sin embargo sobre los destinos usos y objetivos de la renta de garantía de ingresos a la que destinamos los vascos cuatrocientos treinta y cinco millónes de euros

ahí no hay nada que investigar nada que vigilar y nada sobre lo que reflexionar lehendakari por si fuera poco su consejero dijo

y según los propios cálculos de su ejecutivo es decir los suyos los de su gobierno perdieron cincuenta y tres millónes de euros por cobros indebidos

no es relevante perder por fraude cincuenta y tres millónes que es mucho más que el presupuesto que se destina para las ayudas a familias con hijos

los vascos somos solidarios como los que más sí pero los vascos somos solidarios y justos y lo que no nos gusta es que nos tomen el pelo

me da igual de donde venga de donde sea porque ese no es el debate

es cuidar el dinero de todos y repartirlo bien ser como reclamamos los populares vascos

y justos por eso le decía lehendakari que es necesario innovar en la gestión pública en su gobierno corregir estas derivas y racionalizar el gasto público algo para lo que serviría la ley municipal llevamos treinta y cinco años esperando esta ley reclamando esta ley lo que confío es que haya sensatez cordura y voluntad para acordar y pactarla en breve y que no se desvirtué

contra el modelo foral lehendakari creo que su gobierno

y debe hacer más mucho más y después de lo que hemos escuchado esta mañana muchísimo más zure eginkizuna lehendakari jauna

con la limitación del gasto y del endeudamiento para hacer más y ese más no está ligado exclusivamente a la inversión sino al liderazgo y a la acción a la acción para ir transformando nuestro tejido industrial básico y vital

va saliendo adelante en este mundo tan competitivo exigente tecnológico y abierto

que no va a poder absorber lehendakari el volumen de empleo necesario a la acción que le pedimos también

no ha sido capaz de enfrentar no ha sido capaz de afrontarlo lehendakari

que ahí está una de las claves una de las claves por las que no podemos ir al ritmo que nos gustaría creando empleo

desde alemania hasta españa todos los líderes han sido capaces de alcanzar un acuerdo social a pesar de las dificultades con los sindicatos y usted lehendakari para cuándo una negociación colectiva liderada por usted y su gobierno

también hay que decirlo que algún líder sindical vive absolutamente ajeno a todas las transformaciones que estamos viviendo pero no cree que es ahí donde debe fajarse en la dificultad ni una sola palabra en el discurso suyo de esta mañana

sin cambios significativos y de calado a la visión

euskadi debería ejercer su influencia y comprometerse en el apoyo de una euroregión

la cuestión no es tanto como rentabilizamos sino como creamos un área de influencia alrededor de euskadi como lideramos la euroregión del eje atlántico en el cantábrico y yo me ofrezco a ello lehendakari yo me ofrezco a ello para remar con ese objetivo aprovechando la influencia

en este sentido tenemos que ser capaces de consensuar políticas en el país vasco que representen los intereses de los vascos en españa y en europa y ahí también lehendakari

para convencer a otras instituciones le propongo lehendakari toda la colaboración del partido popular para lo siguiente para alcanzar un acuerdo social por el empleo

le propongo lehendakari una reducción de costes imputables a la ciudadanía porque tenemos unas estructuras administrativas vascas desorbitadas y sobredimensionadas

en un sistema europeo de integración no podemos tener islas educativas

atraiga y salga cuenta con nuestros esfuerzos para mejorar

extranjera en el país vasco si algo tengo claro lehendakari es que euskadi es afortunadamente más ambiciosa que usted y su gobierno

generando las condiciones para una mayor inversión en empresas en el país vasco para eso es fundamental garantizar una estabilidad política e institucional

precisamente es usted la desconfianza que usted genera con sus nuevos estatus la indefinición de un modelo de país que para nosotros es este en el que vivimos

y adaptarlos a nuevas realidades aunque eso sea rehacer el pacto fiscal no pasa nada y concluyo lehendakari la sociedad

crear un nuevo inicio y para mí ese nuevo inicio tiene que ver en cómo reforzamos los lazos comunes entre diferentes cómo vamos a enfrentarnos juntos a las fuerzas de la desigualdad la división y el odio que no dejan de desintegrar nuestras sociedades

no existe ninguna garantía de que la historia haya tomado parte por la libertad o de que la democracia vaya a prevalecer

no solo defender la democracia sino reivindicar sus virtudes euskadin konfiantza jartzeko ordua da

euskadik iragana baino etorkizun hobea izateko baldintzak sortu ditzakegu y es una necesidad lehendakari que superemos nuestro pasado

y el recuerdo permanente de quienes fueron asesinados y eso es incompatible con satisfacer a todos porque sus responsabilidades no fueron las mismas y en esto más que nunca no es posible dejar contentos a todos porque no todos están

no están al mismo nivel los inocentes y los causantes algunos entramos en política porque la reivindicación que necesita la democracia

sino la de la acción de nosotros depende pero de usted sobre todo crear las condiciones para que euskadi tenga futuro en la vida de los jóvenes vascos y estos un futuro en euskadi

esperaba algo más que diagnósticos lehendakari instalarse en la comodidad como ha hecho hoy

es la hora de la confianza en euskadi para generar esa confianza no basta con instalarse en la comodidad y no hacer ruido como usted lo ha hecho esta mañana se necesita valentía liderazgo y claridad claridad para concretar su modelo de país usted ha venido a este debate

nos lo deja a los vascos sin esa concreción sin que los vascos sin que los que nos rodean sepan qué modelo de país tiene el gobierno vasco

habrá confianza y seguridad y la confianza y la seguridad es lo que necesitamos para afrontar con madurez el futuro

hoy los vascos son más pobres la renta media

pero los trabajadores cobran menos no se crea empleo estable

mayoritaria en la sociedad de que los jóvenes actuales vivirán peor que la generación anterior y usted hace una huida hacia delante lo deja todo para el dos mil quince o el dos mil dieciséis y la desigualdad está aquí en euskadi los parados están aquí el desempleo crece aquí en euskadi y los socialistas creemos que nuestro principal reto debe sanar las heridas de esta crisis este va a ser nuestro esfuerzo fundamental para eso aquí en euskadi tenemos instrumentos

y los que permiten una mejor redistribución de la riqueza y creemos lehendakari que su gobierno es poco audaz es quejica y victimista y ha asistido casi paralizado a esta degradación de los pilares de la euskadi solidaria y cohesionada

durante décadas ha presentado múltiples planes pero cuáles son los resultados cómo ha administrado una recaudación tributaria superior a la prevista en el primer semestre estamos en septiembre y muchas de las cuestiones que ustedes y nosotros firmamos están todavía en el cajón

sí insuficiente para los socialistas pero mucho más coherente y más progresiva y con efectos reales en la recaudación de este año nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso cumplan ustedes con el suyo y no les vemos esfuerzo en la lucha contra el fraude queremos que ustedes actúen ya cada año nos jugamos dos mil quinientos millónes de euros en esta batalla

políticas de choque para corregir la desigualdad necesitamos estimaciones ciertas necesitamos incluir en los próximos presupuestos los que no tienen quienes

y necesitamos objetivos también creemos que si se ponen en marcha todas las medidas ese fraude fiscal puede reducirse al menos a la mitad en cuatro años y con esos recursos activar el empleo no aceptamos que no llegue para todo gobernar es priorizar y poner las prioridades del gobierno donde están las prioridades de la gente

debe organizar la formación de miles de desempleados que no ven oportunidad de salir de su situación apoyar a quienes arriesgan en sus empresas impulsar la innovación favorecer nuevos empleos de calidad de futuro en condiciones dignas eso es lo que hay que hacer no decir lo que dijo su portavoz

ingresaban en el desempleo y decir que la tendencia era positiva eso es una frivolidad para dar soluciones le ofrecimos hace un año actuaciones concretas y el balance

no hay impulso anticíclico en investigación y desarrollo en el año dos mil doce euskadi lideraba

la que hizo el gobierno que le precedió puede decirnos dónde está

hacen perder el tiempo a los que esperan que ustedes concreten el programa de retorno a los jóvenes en el exterior y siguen sin entender la importancia de los nuevos nichos de empleo

desconocemos también cuantos emprendedores se han acogido al plan de capitalización de desempleo y dónde está el programa específico para empresas de menos de veinticinco trabajadores

usted contaba con los ingresos que proporcionaba la reforma fiscal que mi grupo apoyó este es su balance en materia de empleo lehendakari siguen dejando pasar el tiempo

sin ambición de país un gobierno que ve pasar la vida por la ventana que desde allí ve a los autónomos pero no les acompaña a sus proyectos

eso lehendakari son autónomos que abren persianas y cierran porque no les acompaña su gobierno un gobierno que observa impasible desde su mirador como aumentan los falsos autónomos

para ganar la mitad y seguir trabajando en lo mismo en la misma empresa y ante eso su gobierno solo dice que eso depende de madrid hori da

a propuesta de mi grupo acordamos un plan de empleo para la administración vasca para atender todos los servicios públicos

estamos en septiembre cuál es el plan para el relevo generacional cuántas opes va a convocar en dos mil catorce o se conforma solo con la de la ertzaintza que ya llevaba convocada dos años

ope de radio euskadi que solo sirve para destruir empleo existente no se sorprenda por la conflictividad en la administración ni se escude en responsabilidades ajenas tenía incluso un mandato parlamentario y también lo han incumplido hauxe bera zure etxean gertatzen bada

contrata con empresas privadas en las condiciones que se ponen se pueden exigir unos mínimos de decencia laboral de seguridad en el trabajo de dignidad salarial y de horarios humanos creación de empleo calidad y garantía en la prestación de los servicios públicos eso es lo que nos va a dar cohesión eso es lo que nos puede hacer recuperar el tiempo perdido

en esta larga y profunda crisis eta orain hitzarmen sozial bat proposatzen dituzu orain

ez bestea los socialistas siempre hemos estado y estaremos en los acuerdos estratégicos que han hecho de euskadi cohesionado en la extensión de la sanidad universal pública y de calidad en la garantía de una educación para todos con independencia del origen o de la situación económica

desde el plan contra la pobreza que se hizo hace veinticinco años hoy queremos que todos los desajustes que pueda tener el sistema se corrijan para hacerlo

en el acuerdo que firmamos con ustedes hace un año figuraba la creación de un fondo interinstitucional para la cohesión y calidad del sistema vasco de servicios sociales y de inclusión para nosotros ese fondo es estratégico

sabemos ya las consecuencias del envejecimiento de la población las nuevas necesidades de atención y las dificultades de la conciliación no se trata de dejar sin apoyo a quienes tienen derecho a quienes tienen derecho a recibirlo se trata de atender a todos los que lo necesitan

sea eficaz evite que nadie se aproveche pero que nadie que lo precise se vea excluido igual que hacemos en sanidad igual que hacemos en educación se trata de hablar de invertir en todos nosotros de invertir en innovación en serviciossociales de mejorar la atención domiciliaria de coordinar los servicios sociales sanitarios y de vivienda se trata de fortalecer a las organizaciones del tercer sector de crear nuevos puestos de trabajo en ese área es decir

genera nuevos ingresos porque por cada euro público destinado a servicios sociales se crean dos de riqueza y genera empleo unos veinticinco puestos de trabajo por cada millón de euros invertido

para eso queremos los recursos públicos aléjese del debate sobre la suficiencia de fondos eso es para quienes en el sistema público pero no nos quedamos con ese planteamiento estratégico tenemos que atender las urgencias de hoy mismo las que hay este veinticinco de septiembre

las que ustedes nos han venido diciendo que no existen porque nuestro modelo no tiene parangón en el resto de españa mi grupo ya le ha pedido que utilice los excesos de recaudación

porque los veinte millónes presupuestados no son suficientes este gobierno no ha tenido problemas para encontrar veintiuno millónes de euros no presupuestados para otras cosas los ha encontrado para pagar a escote entre todos los vascos por ejemplo la multa que nos ha impuesto europa porque unos dirigentes nacionalistas muy cabezones decidieron torear a europa con las vacaciones fiscales y nos dice que no hay para emergencias sociales

en el pleno monográfico que tendremos dentro de un mes porque en este curso los socialistas vamos a centrarnos en defender la euskadi solidaria y cohesionada de la que tanto hemos presumido hasta hace poco

y para esa cohesión sobran los que enfrentan las necesidades

defendemos una planificación estratégica del conjunto del sistema social y eso supone hablar de empleo de vivienda de educación y de sanidad de todo a la vez

que en el último sociómetro su gobierno tuviera mucho interés por saber si los ciudadanos están dispuesto a pagar de su bolsillo determinados servicios sanitarios hoy gratuitos

continuando con el departamento de salud qué pasa con lo acordado y presupuestado en el hospital de eibar

a qué elecciones esperan para sacarse una foto allí y el hospital universitario de álava para cuándo el nuevo plan director para cuando el desarrollo de santiago que pactaron con nosotros

porque su director médico y su gerente están imputados por razones laborables por qué la compensación por el repago para las rentas bajas que conseguimos arrancarles

por qué no hemos visto en los medios de comunicación campañas de divulgación de este derecho y sí informaciones pagadas a mayor gloria del consejero ez dugu konfiantza ezta ere

apuestan por el trilingüismo para todos o por ese plurilingüismo que no acaban de definir pocas razones tenemos también para fiarnos de su política de vivienda la nueva ley estará aprobada previsiblemente en semanas próximas y van a tener que aplicarla

a que busquen acuerdos queremos que ustedes que tienen la responsabilidad de gobernar estén en el acuerdo si no lo hacen será porque prefieren el parcheo y planes cuyos objetivos no se cumplen nunca y si optan por el parcheo en lugar de por el derecho será para cobijarse otra vez bajo la sombra del pp

el victimismo y huir de su responsabilidad esperaran a ver si el gobierno de rajoy recurre la ley la paraliza y entonces sí aparecerá el pnv que defiende el autogobierno y a los débiles nosotros queremos utilizar todas nuestras competencias para ese derecho

oinarriak adosteko legezko arauei jarraiki para que quede clara nuestra posición

vascos a secas vascos no nacionalistas vascos preocupados por contar con un marco que dé seguridad a los derechos sociales de los ciudadanos y los socialistas queremos cambiar la constitución queremos cambiarla porque no queremos que ni la sanidad la educación o la vivienda se pueda ver cercenado por ningún gobierno ni el de rajoy ni el suyo que intentó también hacer lo mismo hace un año y medio

y queremos cambiar la constitución entre otras cosas porque en efecto el esquema territorial que se dibujó necesita adaptarse a la nueva realidad de españa y de todas las comunidades

y situar a euskadi en esa red y es ahí donde queremos encajar la actualización de nuestro autogobierno no estamos en una ponencia para entretenernos mientras otros desde la indefinición

o votan el derecho de autodeterminación en este parlamento mientras reclaman pactar con la corona los socialistas estamos en la ponencia que pactamos con el pnv para conseguir que el autogobierno

no deseadas mediante la legislación básica del estado esa es nuestra posición el gobierno vasco no va a encontrar en los socialistas o una excusa para ningún otro objetivo que no sea ese trabajaremos solo para mejor el autogobierno al servicio de los ciudadanos

y creemos que en este momento de revisión completa al que nos vamos a someter en españa todos debiéramos estar a la altura de nuestra responsabilidad el debate constitucional

y en él deben participar todos aquellos que tienen propuestas sobre lo que cambiar y no vale quedarse en un rincón así que si ustedes tienen otras cosas en la cabeza como su derecho a decidir zanje los trabajos en la ponencia y hagan su propuesta nosotros hemos sido claros

si ustedes creen que la política debe ser útil ofrecer soluciones no gestionar frustraciones y dar salida a los problemas de los ciudadanos dejen los globos sonda y aquí y en madrid busquen acuerdos no gasten el tiempo con señuelos y nos emplacen a divagar tenemos cosas

para los socialistas las reformas institucionales pendientes no se agotan solo en la constitución y en el estatuto ustedes siempre se sienten cómodos en ese debate porque les permite quejarse de otros pero aquí tenemos mucho por hacer nosotros tenemos prisa con la ley municipal porque es una ley que ofrece a los ayuntamientos un marco legal seguro y esa norma supone de hecho una modificación de la lth y le recuerdo que esa ley debe estar reformada para diciembre de dos mil quince según el pacto que suscribimos hace un año

y aún no tenemos noticia de que el gobierno haya empezado a trabajar en esa reforma

los socialistas traeremos una proposición de ley de modificación de la lth para que pueda ser tramitada debatida y acordada antes de que finalice el dos mil quince

parece que ustedes tenían otros planes y otras propuestas para el dos mil quince pero que sepan ya que la nuestra en ese ámbito es trabajar sobre la ley municipal y la reforma de la lth

y encajamos aquí también la reforma institucional de la ley de administración pública la que acaban de remitir

esa ley debe perfeccionar la transparencia de la administración esa de la que usted presume del índice de transparencia que es otra cosa que el que heredó del gobierno anterior y visto lo visto

en los últimos tiempos líos que no parece que ha sabido solucionar a tiempo ceses de directivos en empresas públicas contrataciones de publicidad institucional indebidamente contratada lehendakari debería tomar las riendas y poner orden porque esto le daña no solo a usted y a su gobierno sino que daña al ejercicio de la política

todos los consensos labrados con tanta dificultad y con tanto esfuerzo se han ido deshilachando

se deshace desde la publicidad y el interés partidario eso ha ocurrido y repito que lo lamentamos si quiere recuperar el consenso los socialistas estamos dispuestos si no tampoco alentaremos la discusión pública ni alardearemos de diferencias pero sí seremos contundentes cada vez que usted alimente sus errores

donde haya que desandar el camino ni en la polémica permanente nos quedamos con el trabajo ya

esperemos que la ley de creación del instituto de la memoria salga adelante como lo ideamos conjuntamente y le propongo recuperar el lugar que en su día compartimos para avanzar y convivencia sin un paso atrás concluyo ya lehendakari

formar un gobierno en minoría comenzó fracasando se vio obligado a buscar acuerdos y los encontró en quienes siempre hemos estado en la construcción de este país en la construcción social e institucional de euskadi se vio forzado

que o no cumple o solo cumple a empellones los socialistas no vemos en usted convicción en ese acuerdo no nos inspira confianza porque todo lo acordado entonces sigue siendo válido pero debe reflejarse en los presupuestos y cumplirse en los plazos no lo hace lehendakari los socialistas construimos acuerdos que sean útiles a los ciudadanos y vamos a evaluar esa utilidad y el balance que hagamos sobre los acuerdos pasados va a ser determinante para lo que hagamos en el futuro mientras tanto seguiremos impulsando todos sus contenidos así como todas las iniciativas

social de la euskadi agrietada por la crisis la adaptación de toda nuestra arquitectura institucional para ponerla desde la transparencia al servicio de los ciudadanos y queremos que lo hagamos en este curso que empieza que sirva

que buscan una oportunidad de empleo para acabar con la precariedad salarial para aliviar la situación de los sesenta y cinco mil adultos que acuden a la renta de garantía de ingresos como refugio de subsistencia

para apoyar a los jóvenes que quieren emprender un proyecto de vida autónomo para ayudar a esa mitad de hogares vascos que hoy no llegan a final de mes queremos

atienda a los dos millónes de vascos que dependen de su gobierno y de este parlamento usted sabrá si quiere contar con nosotros para esas tareas y para esas prioridades

en este último año muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

eta galbidera ez eramateko ardura politikoaz lo que está sucediendo a nuestro alrededor es demasiado importante como para no tenerlo en cuenta escocia cataluña la crisis de la reforma franquista en el estado español

que se puedan abrir para nuestro pueblo todo ello es demasiado importante como para dejarlo para dejarlo marchar no podemos seguir como si aquí no pasara nada no podemos seguir tranquilamente chapoteando en el mar de la mediocridad donde todos y todas nos sentimos más o menos cómodos resguardados en la irresponsabilidad dejando que pase el tiempo echando a perder lo que queda de legislatura que debería ser una legislatura clave para el futuro de euskal herria como país sin embargo tenemos el privilegio de estar aquí este parlamento no es ni mucho menos el ombligo del mundo

no estamos mal situados para ayudar a llevar a nuestro pueblo a otro estadio a un estadio de paz definitiva de verdadera convivencia democrática y de justicia social el privilegio de poder incidir en esta situación política tan especial

la responsabilidad de hacerlo de hacerlo y acertar porque en primera persona del plural no podemos fallarle a nuestro pueblo ni condenarle a la apatía política y el hastío

sus representantes políticos volvieron a confundir lo urgente con lo importante behin areto honetan bertan izandako eaj eta eh bilduren arteko

ala nahi ez vivimos una nueva etapa política en europa una etapa donde cada vez va a ser asumido de una forma más natural el derecho a decidir de cada sociedad es decir el principio democrático de que cada comunidad puede y debe decidir cómo organizarse internamente

con sus vecinos y quien se posicione en contra del derecho a decidir aquí como en cataluña se queda fuera de juego se queda políticamente fuera de juego

y alguien se cree que hace cuarenta años sin ruido de sables de fondo se habrían hecho esos acuerdos más bien

hoy queda más reforzada que nunca la necesidad de una ruptura eso sí exquisitamente democrática con ese estado que ni en estos cuarenta años ni en otros cuarenta siglos va a tener disposición alguna a reconocer a euskal herria como sujeto de decisión por eso

todos y todas sabemos que la bilateralidad con madrid es imposible igual que la soberanía compartida porque para compartir hay que tener y ellos ellos

prozesu eratzailea izan beharko da hau da atendiendo a nuestras propias realidades necesitaremos un proceso constituyente en ipar euskal herria otro en nafarroa

con diferentes etapas con diferentes ritmos con diferentes consultas también con diferentes preguntas seguramente pero mismo destino hacer a la ciudadanía de euskal herria al conjunto de la ciudadanía de euskal herria única dueña de su futuro político siempre por vías estrictamente democráticas

es la consigna de este gobierno y un arte que domina casi a la perfección no se puede pedir que la dinámica política por el derecho a decidir sea liderada

y luego crear una ponencia en el parlamento para pasar el rato durante un curso y medio sin debatir ni proponer nada sobre el derecho a decidir proposamen bat

queremos el derecho a decidir para el bien común porque queremos desarrollarnos plenamente como sociedad con un modelo económico social educativo cultural y lingüístico propio según las necesidades de la ciudadanía vasca azkenaldian

para que siga funcionando el actual modelo económico o cambiamos el modelo económico según las necesidades de la gente y cuando hablo de la gente me refiero sobre todo

en otras condiciones pero que se ven obligadas a pedir ayudas sociales para subsistir me refiero a quienes más están sufriendo esas personas trabajadores y trabajadoras vascas

son imprescindibles no podemos dejar que se hundan en esa grieta social jaurlaritza gaur gaurkoz lehenengo aukeran dago

propaganda merkea murrizketa sozialak aplikatzen diren bitartean el gobierno nos acostumbra a presentarnos varios planes por semana cuando acaba el eco mediático de uno empieza otro una vez más si no haces por lo menos esa es la consigna y son muy buenos y mientras tanto recortan sin escrúpulos los servicios públicos recortan los servicios sociales y recortan la esperanza de tanta gente bai murrizketa da

solo podemos esperar miseria para euskal herria y un crecimiento de las desigualdades sociales cada vez mayor por eso necesitamos decidir aquí nuestro modelo económico

decidir aquí nuestras propias políticas sociales a eso en eh bildu le llamamos derecho a decidir para el bien común derecho a decidir cómo queremos vivir para que todas y todos vivamos con dignidad en este país madrildik

aunque algunos partidos políticos no quieran que el proceso de resolución del conflicto avance

no les va a aceptar la parálisis por eso nos vamos a mover vamos a dar un paso para que este parlamento sea un instrumento más en este proceso de resolución

va a continuar va a continuar en cada lucha social de cada pueblo y cada barrio de euskal herria en toda dinámica popular a favor de los derechos de los presos políticos vascos vamos a continuar en la calle

pero también en cada institución también en esta institución vamos a seguir siempre con la misma mentalidad con el país a la espalda dispuestos y dispuestas a compartir esta vía vasca a la soberanía con quien quiera venir eta gauza batez ziur gaude egingo dugun guztia gutxi

a cuenta de que europa está estancada y no crece y está acomodada

surge el debate sobre el sistema de protección social ya sé que es un tema vidrioso y al parecer políticamente

yo creo que tendríamos que ser conscientes o al menos quisiera

intergeneracional a la hora de tomar las decisiones nosotros en este parlamento o en otros ámbitos ejecutivos

a esas futuras generaciones que nos van a seguir la que nos siga y la que siga

y las decisiones que tengamos que adoptar tendrán que ir en la línea de garantizar un sistema sostenible también en el tiempo porque lo demás lo que vamos a transmitir y ellos van a heredar máxime si se hace

desde el endeudamiento lo que vamos a transmitir y van a heredar es un sistema que se va a caer y tenemos el mejor sistema

comparativamente con todas sus dificultades presupuestarias de los programas etcétera etcétera pero una reflexión sobre esta materia yo creo que urge

o durante una campaña electoral pero un político que atienda a las necesidades de presente y también quiera proyectar ese sistema

y el lehendakari y su gobierno aborda esa reflexión por lo tanto modelo vasco de crecimiento que tiene que pivotar sobre la competitividad de esas empresas que abordaron una primera fase en línea de eficiencia y que en este momento en esa línea de transformación también apuestan por la innovación

y el sector servicios evidentemente y si a esto y a estas vamos a decir a estos tímidos datos de recuperación económica

acuerdos interinstitucionales o políticos yo creo que redundaría en beneficio de todos con independencia

de quién sea la cabecera política de qué institución yo creo que en una perspectiva de país y mirando a la propia sociedad

además de eficaz y productivo el que intentáramos acuerdos interinstitucionales o políticos en esta dirección horregatik

egunekoa blokeatu la gente dice bien se repudia al pasado

se teme el futuro porque abre unas puertas políticas entonces qué por qué han optado pues bloquear el presente se bloquea el presente

si el pasado que ha sido de destrucción y de vulneración sistemática de derechos humanos y es un escenario afortunadamente superado con el principio de respeto de los derechos humanos de todas las personas

no es una unidad de medida clave también para hacer el recorrido retrospectivo del pasado ese mismo principio de defensa de los derechos humanos y ver dónde están las vulneraciones

identificar hacer una memoria justa no parcial

vulneraciones de derechos humanos entonces hay un miedo a abordar el pasado y claro se teme el futuro porque el futuro político se abre y posibilita

eran imposibles porque existía también en la sociedad vasca

que evidentemente impedía una unidad de acción política por

todo eso ha cambiado o puede cambiar pero las cosas no suceden

es que no suceden por eso yo creo que para que se pueda rehabilitar

hace falta primero una perspectiva y dimensión humana para analizar todo lo que ha sucedido

y altura de miras porque el gobierno se plantea y el grupo comparte primero vamos a acercar en el tiempo lo más posible

una nueva política penitenciaria a través del instituto de la memoria una memoria completa sin lagunas con verdad y justicia el programa hitz eman o gertu de las víctimas

vectores de trabajo está en marcha entonces yo creo que el lehendakari

incorporan ustedes cierta concertación acuerdo

o sigo solo con el plan porque va a seguir haciendo

afrontar los retos y desafíos y ha sido valiente ha dicho que tiro para delante y hagan ustedes

en transitar con su proyecto político del pasado

y decide bloquear el presente pero es que el tiempo sigue las cosas marchan y por eso sí creo que hace falta también actualizar

no es lo mismo dejar la violencia por un imperativo o requerimiento estratégico

no es lo mismo se entiende no

no es lo mismo hacer un uso instrumental de la democracia que participar

de esa democracia y no es lo mismo porque además de desterrar o abandonar la violencia

exige desmontar toda una arquitectura impositiva todo un andamiaje impositivo que como proyecto político de la izquierda abertzale ha convivido en relación a un escenario de violencia

lo vemos así no será toda la verdad no será la verdad absoluta pero lo vemos así y cuando hablamos de lectura crítica del pasado

ya dejé hace mucho tiempo de instar a que se hiciera lo hacemos

porque quisiéramos edificar un futuro compartido en línea de acción democrática porque

determinados dirigentes con viaje a escocia o sin él han reflexionado e instaban a urkullu que nos diéramos prisa que españa no nos va a atender

cree que debe ofrecer alguna explicación porque si alguien ha estado esperando

durante más de treinta y cinco años ha sido la sociedad vasca la sociedad vasca ha estado esperando y desde luego el partido nacionalista vasco se incluye dentro de esa sociedad vasca cree la izquierda abertzale

alguna explicación del retraso para la incorporación a las vías políticas y democráticas definitivamente o no por eso digo que no es lo mismo

a la violencia como lo ha hecho eta por un requerimiento estratégico

que hacerlo por esa invalidez democrática no es lo mismo horregatik etorkizunean eraiki beharrekoa eraikiko dugu

aclarar en primer lugar arantxa quiroga presidenta y portavoz del grupo popular

guión de campaña que hace que suceda lo que suceda hay que interpelar al partido nacionalista vasco para que

su planteamiento independentista o no renuncie al mismo el partido nacionalista vasco desde su origen constitución

aspira a la constitución de un estado vasco independiente en europa a partir de ahí el partido nacionalista vasco ha hecho

se hace como una reserva de derechos de la que hemos hablado en la ponencia precisamente

a partir de ahí el partido nacionalista vasco participó junto con eusko alkartasuna y ezker batua en la aprobación

se apuesta por consagrar el sujeto político pueblo vasco y derecho a decidir y se hace un ejercicio concreto de ese derecho a decidir con espacios y competencias compartidas con el estado español veo que no se lo han leído

eso son los ejercicios concretos que el partido nacionalista vasco ha hecho ahora si me pregunta cuál es nuestra prioridad la prioridad es

político y económico de este pueblo y para eso hay que dotarle de las herramientas más adecuadas porque la soberanía política y la económica son dos caras de la misma moneda no estamos hablando del derecho a decidir como un ejercicio evanescente romántico

de los ciudadanos y ciudadanas de este país por supuesto configurando un sujeto político que tiene derecho

partiendo de una sociedad cohesionada y veo que su pensamiento incluso va por detrás

de los cuadernos de pensamiento políticos de faes que dirige

porque en esa previsión de lo que podía suceder en escocia

hay reflexiones habrá más pero hay unas cuantas en una dirección

que con toda probabilidad se llevara a cabo tal tal tal habla de un tiempo

remota o una perdida colonia vestigio de un glorioso pasado imperial escocia forma parte de la isla de gran bretaña y representa

más de un treinta por ciento del conjunto del territorio nacional y dice quizás lo más sorprendente

de la realidad política es que tal declaración oficial acompañada también de su correspondiente hoja de ruta no se construye sobre la base

sino mediante una apelación sencilla directa e inmediata al principio democrático esto es

hombre el lehendakari ha hecho esa apelación al principio democrático es que dicen quieren ustedes el método escocés el método escocés

no hay un acuerdo en la situación de fondo cameron es unionista salmon es independentista no se ponen de acuerdo qué es lo que acuerdan que decida el pueblo pero no decide el pueblo galés

ni el alemán ni el español decide el pueblo escocés eso es la aplicación del principio democrático por lo tanto yo le diría clarísimamente en vez de insistir tanto usted requiere

clarificación por parte del partido nacionalista vasco sobre esta cuestión

el compromiso del partido popular de rajoy y si arrastra a pedro sánchez de paso mejor

este no este parlamento en primera instancia sí la ciudadanía vasca decida y llegamos a un acuerdo a la pregunta y si quiere usted

se pregunta pero no me haga trampas porque el planteamiento que me está haciendo o bien es cínico o es infantil o las dos cosas

porque no venga digan ustedes si son independentistas aclárelo usted no se ha leído el programa del partido nacionalista vasco

que llevó a este grupo parlamentario al partido nacionalista vasco a tener veintisiete escaños pues está entre la página doscientos cincuenta y uno y doscientos cincuenta y siete

accedan accedan al texto y miren lo que el partido nacionalista vasco dice

directo de independencia está hablando de la configuración y reconocimiento del sujeto político y el derecho a decidir y pactar el ejercicio

la articulación política del conjunto del pueblo vasco está en el programa electoral

que la sociedad vasca en su conjunto debe ser dueña de su propio destino y aspira a que los ciudadanos y ciudadanas de todos los territorios vascos se les reconozca el derecho

de relaciones que desean tener entre ellos incluida la posibilidad de conformar un marco institucional unitario si esa es la voluntad mayoritaria y sigue y sigue

cinco compromisos que nosotros entendemos y entendíamos democráticos y el primero de ellos curiosamente es el que aparece en los cuadernos de pensamiento de faes es el principio democrático

antes de hablar de si vamos a la independencia o no compartir que el principio democrático más básico exige dotar a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante

clara de esa voluntad saben ustedes lo que están consiguiendo por ejemplo en cataluña yo no sé si el nacionalista catalán más optimista

que en tres años solo en tres años el derecho a decidir del pueblo catalán fuera un elemento estructurante de la sociedad catalana

y lo es porque con independencia de que uno quiera la independencia o un estado con no se qué soberanía compartida

votar y se les está negando la posibilidad y en este momento el derecho a decidir

en cataluña es un elemento estructurante de la sociedad catalana a partir de ahí vuelvo al derecho a decidir y la vía la vasca porque claro esto de que ahora

a que alguien pusiera en off la estrategia político militar

que nos iba a traer la independencia y la autodeterminación previamente y no se sabe si el socialismo después

que ahora se nos diga directamente de la noche a la mañana señores esto arranca

y vamos a una confrontación democrática piano piano gauza bat

se ha caracterizado en algo y por algo

con ese acompañamiento crítico que haya podido mantener con una determinada organización